egun on guztioi la proposición no de ley que tengo el gusto de presentar en nombre del grupo socialistas vascos es muy fácil de explicar tiene como objetivo mantener el número de ocho mil efectivos en la policía vasca

por los gobiernos central y vasco en el seno de la junta de seguridad en las últimas semanas estamos asistiendo a pronunciamientos y debates sobre cuál es el papel

también repetido en los últimos días sobre si realmente estamos asistiendo a ese tiempo nuevo o no creo que la apuesta mayoritaria es que se debe impulsar una mayor presencia

en las calles de euskadi que es necesaria una mayor visibilidad

y estoy citando palabras textuales de la propia consejera por lo tanto creemos que no es de recibo que limitemos

en las calles de euskadi teniendo en cuenta que el haber acordado

entre otras cosas se corresponde para que el gobierno central colabore en la financiación del coste

los socialistas vascos partimos del hecho de que la ertzaintza es nuestra policía civil democrática e integral no creemos que es el momento de redefinirla con calificativos que desde nuestro punto de vista siempre la han caracterizado por ello estamos de acuerdo en que hay que aprovechar cualquier circunstancia

de la policía vasca para conseguir este objetivo consideramos que es una condición indispensable

cuente con todos los efectivos posibles todos aquellos que como he dicho antes están inscritos o están circunscritos en ese acuerdo de la junta de seguridad y cofinanciados por el propio estado volviendo a los ocho mil

esta es una policía reciente si la comparamos con otros cuerpos de nuestro entorno pero aunque a alguno le parezca que fue ayer hace ya más de treinta años

esto lógicamente obliga a un relevo generacional que hay que tener previsto y creo que estaremos de acuerdo que este relevo solo se puede realizar mediante la incorporación de nuevas promociones de ertzainas

nos dicen que este año estamos en ese umbral de los ocho mil efectivos y que en el año dos mil trece a lo largo de este ejercicio

agentes y que en dos mil catorce lo harán otros setenta y dos

denominadas vegetativas que hay que tener también previstas cada año nos resulta que a finales de dos mil catorce tendríamos doscientos cincuenta y siete efectivos menos en la ertzaintza consideramos por tanto

esta situación y tomar las medidas para que no se produzca este déficit de efectivos todo esto lo digo sin tener en cuenta lo que la propia consejera y los representantes de los grupos políticos que estábamos ayer presentes en

una convocatoria sindical para hablar sobre el modelo de policía y que

que se proponía por parte del sindicato convocante

que están considerados en la segunda actividad la convocatoria urgente de una ope es la única manera de prevenir la situación que nos podemos encontrar en un espacio de tiempo no lejano en un espacio de tiempo inmediato para analizar la propuesta que está inscrita la proposición no de ley que presentamos nos basamos en tres elementos

hasta la incorporación definitiva en el cuerpo tenemos que dar un plazo de entre dieciocho y veinticuatro meses para completar todo este proceso

entre dos mil quince y dos mil dieciséis se sumarán con los cálculos de sumar jubilaciones más bajas vegetativas al déficit otros trescientos sesenta efectivos por lo que si retrasáramos la convocatoria de esta ope la acumulación

haciendo progresivamente mucho mayor y la tercera razón

ope con números excesivos de plazas dado que la academia de arkaute

de menos de trescientos efectivos además si tenemos en cuenta que la academia de arkaute

a raíz de una ope tiene que también atender a la formación continua

en servicio y también a la formación continua de las policías locales y también a la formación continua del personal que se dedica a emergencias por lo tanto son razones que obligan a tomar en serio comprometer la convocatoria de una oferta pública de empleo

incluso como nosotros décimos en la proposición no de ley que se convoque en este mismo periodo de sesiones además si el compromiso del gobierno es el mantener los ocho mil efectivos pactados en la junta de seguridad creo que no hay otra solución para cumplir este compromiso que el convocar esta ope que nosotros proponemos porque señorías no vaya a ser que este gobierno que tiene como uno de sus objetivos

está plasmado por ellos mismos en el sentido de que quieren un repliegue de las fuerzas de seguridad que tienen ámbito estatal a ver si lo que va a conseguir es un repliegue efectivo y real de la propia ertzaintza de nuestras calles

porque no ha sido posible comprometer al grupo nacionalistas vascos al grupo que apoya al gobierno a un compromiso en el que se refleje que en este año

pero flexibilizábamos nuestra postura hasta decir que en este año se convocara esta ope nosotros creemos que esto es una medida prioritaria

máxime en un contexto en el que

se nos anuncia podemos contar con mayores ingresos

a corto plazo parece ser según ha dicho el propio lehendakari

del presupuesto de esta comunidad autónoma por otra parte esto es algo que nosotros el grupo socialista ya lo preveíamos que podía haber estos ingresos y por lo tanto cuando presentamos esta oferta

proponemos la convocatoria de esta oferta pública de empleo lo hacemos porque consideramos que dentro de las prioridades que tiene que marcar

de plantear y ejecutar un presupuesto esta la oferta pública de empleo consideramos que debe ser de prioridad máxima de prioridad uno por lo tanto

se puedan sumar los suficientes apoyos a la proposición para que salga respaldada y como digo con ese objetivo de que en nuestras calles en las calles de euskadi haya el número de efectivos que le corresponde

el número de efectivos que deben tener un papel de más seguridad para la ciudadanía que deben cumplir

tengan esa seguridad que les corresponde y que además como he dicho antes está ya pactada y está incluso cofinanciada por el propio estado muchas gracias eskerrik asko

auténtico caos hablamos de tasas

más bajas en nuestro ámbito de proximidad y por el contrario tenemos los ratios policiales más altos por habitante de europa occidental hecho incuestionable y que sin embargo ustedes

debate no es posible conocer el número total de policías que actúan en nuestro territorio ni sabemos con claridad cada uno a qué funciones responde funciones solapadas funciones como las de control social injustificadas

como son los delitos ecológicos repito un mapa policial auténticamente caótico se habla de un umbral

docena arriba docena abajo y es que no se puede saber el número total de miembros de la ertzaintza a día de hoy porque no conocemos la rpt

en situación de provisión de servicios en segunda actividad no conocemos los datos concretos para ponernos en marcha en este tema

en base a bajas y jubilaciones irá descendiendo a razón de ciento cincuenta aproximadamente por año acelerándose entorno al dos mil veinte algo entonces que nos muestra que no es perentorio la realización de nuevas

porque vemos más prioritario el realizar algunos otros deberes que a día de hoy no están realizados la ley quince barra dos mil doce de ordenación del sistema de seguridad pública de euskadi está sin desarrollar su decreto

no nos permite conocer siquiera el número de policías municipales su media de edad

laboral no conocemos de cuánta policía municipal contamos estamos en un momento en el que solo tenemos sobre la mesa

un esquema denominado horizonte dos mil dieciséis que todavía no dibuja ni necesidades ni prioridades sino iniciado a discutir ese plan que todavía como digo no es más que un mero esquema de trabajo un plan que por cierto desde nuestro punto de vista ya en vez de racionalizar la estructura de la ertzaintza para que pueda contar con agentes que invertir en proximidad se están realizando maniobras que nos resultan incomprensibles vinculando una cantidad importante de estos ertzainas

que desde eh bildu apostamos porque se reduzca progresivamente hasta incluso su desaparición

en lo que todavía trabajar venimos de un debate presupuestario que parece que quedará en la nada pero sin embargo

líneas rojas en ámbitos básicos de bienestar de la ciudadanía recortes que si se deben de dar en algún sitio eh bildu entendía que debía de ser en adelgazar

alor honetan en definitiva repito un mapa policial

una situación económica y prioridades de presupuesto que son inciertas una realidad absolutamente cambiante como para encadenarnos

con esta fotografía variable a ustedes señor unzalu solo se les ocurre plantear un aumento

sin explicar por qué para hacer qué para destinarlos a dónde

qué realidades qué necesidades o prioridades francamente nos suena a algún tipo de compromiso de tipo clientelar que adoptasen en su anterior responsabilidad y por eso nos oponemos a la propuesta que usted

y sometido siempre al estricto control público perfectamente implicada en la sociedad vasca

rápida y eficaz en su labor policial sin embargo es cierto los esfuerzos propios de su despliegue integral y su desarrollo profesional se han visto constantemente

una de las consecuencias de la existencia de eta ha sido el progresivo y lógico por otra parte repliegue al que se han visto abocada

durante tantos años un repliegue psicológico y físico

en detrimento de un despliegue más funcional operativo

hacia los servicios policiales que reclamaba y sigue reclamando hoy la sociedad vasca

aunque afortunadamente sin conseguirlo ahora con el cambio de ciclo

debemos realizar un esfuerzo de adaptación y fijar claramente hacia donde queremos caminar en la consolidación de esa policía integral cercana eficaz y eficiente

en el plan estratégico ertzaintza horizonte dos mil dieciséis y que debieran ser

el sentido de servicio y la imagen corporativa establecer el plan general de seguridad de euskadi que priorice la actuación preventiva sobre la reactiva impulse la seguridad ciudadana y investigación y que defina un modelo de gestión

que refuerce los servicios policiales de prevención y proximidad con el fin de aumentar la confianza de la sociedad en sus servicios de seguridad con autoridad legítima avanzar hacia una nueva estructura organizativa adecuada a las nuevas necesidades de seguridad optimizando su eficacia y su eficiencia

éxito optimizar la planificación y la gestión de las ertzain etxeak

a través de la mejora continua y racionalizar en definitiva la gestión de los recursos tanto materiales como humanos considerando la sostenibilidad

como referencia y es señorías dentro de esta reflexión estratégica y no al margen de ella donde el debate sobre la dimensión de la plantilla adquiere su sentido pleno es en el contexto de ese plan en el que se van a fijar los ejes y objetivos estratégicos

donde debemos situar también la reflexión sobre el dimensionamiento del cuerpo en el que se fijen no solo los ritmos necesarios de futuras ofertas públicas de empleo

sino incluso para plantear nuevas demandas a la junta de seguridad

siempre como he dicho desde la racionalización de la gestión de los recursos buscando la sostenibilidad económica y social la cuestión señor unzalu no es como decía usted buscar conseguir todos los ertzainas posibles sino todos los realmente necesarios

policial de proximidad eficaz y eficiente

esa es pues la razón por la que la enmienda presentada por mi grupo pretende elevar más allá de un número concreto de agentes el objetivo de la proposición instando por una parte al gobierno a garantizar el número de agentes necesarios y conforme a los acuerdos entre los gobiernos vasco y español en el seno de la junta de seguridad y por otra a garantizar con ello la seguridad de la ciudadanía propiciando la cercanía de los ertzainas a la gente

que es uno de los objetivos fundamentales de la reflexión estratégica antes mencionada como creemos además que la ertzaina es y debe seguir siendo una policía integral y como creemos que la realidad ha avanzado dejando atrás la violencia terrorista

adecuación de las fuerzas de seguridad del estado a las labores correspondientes a su estricto ámbito competencial es algo que debemos poner hoy también sobre la mesa y que adquiere pleno sentido

esencial como policía integral próxima y cercana y por tanto asumimos como grupo junto con el gobierno el compromiso de tomar las medidas necesarias

esos objetivos incluidos en su caso las necesarias ofertas públicas de empleo que los garanticen los ocho mil o aquel número que de acuerdo con la junta de seguridad fuese necesario para

gracias presidenta buenos días a todas y a todos la iniciativa de grupo socialistas vascos
nos plantea y nos explica en su justificación que

puede enfrentarse a problemas de estabilidad en el corto plazo y que si no tomamos medidas podríamos encontrarnos el próximo año con un déficit de ertzainas si tomamos dice

en el seno de la junta de seguridad y por ello el grupo socialistas vascos nos propone por un lado instar al departamento de seguridad a garantizar que la plantilla de la ertzaintza siga manteniendo en los próximos

según los acuerdos alcanzados entre el gobierno vasco y el gobierno central cosa que

nos parece correcto y por otro lado instar al departamento de seguridad a convocar una ope para antes de finalizar el periodo de sesiones con el fin de incorporar

en los próximos meses en este punto nosotros tenemos serias dudas sobre si el asunto es tan urgente como para tener que convocar una ope digamos que ya mismo

económica en la que nos encontramos por su parte el grupo nacionalistas vascos plantea en su enmienda a la totalidad por un lado

el número de agentes que han de integrar su plantilla pero sin concretar el número de agentes

este punto del grupo nacionalistas vascos es aceptable y por otro lado lo que plantea es instar al departamento de seguridad a garantizar la seguridad de los vascos propiciando

a la ciudadanía reforzando su carácter de proximidad respecto a esto de la proximidad y cercanía

de seguridad aquí presente ha venido repitiendo desde que accedió al cargo me gustaría decir algunas cosas y sobre todo una los ciudadanos

se sienten cercana a la policía cuando perciben y comprueban fehacientemente que se ocupa de resolver los problemas de seguridad que la ciudadanía tiene si es así

su trabajo con la cara tapada o con cristales oscuros en sus vehículos o protegidos por la amenaza terrorista esto no ha significado

de la ciudadanía porque los ciudadanos y me refiero lógicamente a los ciudadanos decentes lo que quieren es que realicen la labor que les toca por lo tanto el hecho de que

con la cara tapada o con los cristales de sus vehículos oscuros o protegidos por la amenaza terrorista este hecho no ha significado que la ciudadanía la haya sentido a esta policía

y el gobierno vasco y el grupo nacionalistas vascos en los últimos tiempos vienen insistiendo en que tienen como objetivo subrayar el carácter de servicio público

realizando un gran servicio público ha realizado un gran servicio público siempre que desde las instancias políticas

cosa que también ha ocurrido en el pasado hoy mismo ahora mismo recientemente el portavoz del grupo nacionalistas vascos hablaba de recuperar

ese carácter de servicio público y lo ha desarrollado el departamento de seguridad viene insistiendo en que la ertzaintza sea una policía del pueblo y para el pueblo

pero conviene recordar que la ertzaintza lleva siendo una policía del pueblo

e insistir en esto como permanentemente se hace en que debe ser una policía del pueblo como si no lo fuera ya puede llevar a equívocos que aprovecharán otros

no era o no es del pueblo el departamento de seguridad viene insistiendo

debe estar cerca de las necesidades de los ciudadanos y está bien

ha estado y está muy cerca de las necesidades de los ciudadanos o al menos no deja de estar o no ha dejado de estar cerca porque tenga que ocuparse de luchar contra una banda terrorista sino que el que se haya ocupado

también le ha hecho cercana muy cercana a la sociedad a la sociedad decente me refiero no a los delincuentes

porque percibían y perciben los ciudadanos que esa policía se dedicaba y se dedica a su trabajo en fin no recuerdan ustedes tras el asesinato de miguel ángel blanco las emocionante

que protegían a los malos despojándose de sus pasamontañas porque de los buenos no había nada que temer

les abrazaba una imagen que simboliza lo cerca y lo cercana que los ciudadanos decentes

el departamento de seguridad insiste en

ganar la confianza de la ciudadanía mediante la cercanía la visibilidad la accesibilidad y la disponibilidad hacia las necesidades de los ciudadanos y está bien

cuando estos perciben que esa policía se dedica a realizar el trabajo que en cada momento le toca

física digo todo esto porque observo que este departamento de seguridad parece ciertamente acomplejado y está

en repetir que quiere una policía del pueblo una policía cercana una policía visible y una policía que atienda a los ciudadanos en fin o una policía civil

pero es que esto ya es la ertzaintza la ertzaintza ya es todo esto

ya es una policía cercana ya es una policía visible y ya es una policía que atiende a los ciudadanos vascos

lo recuerde y lo diga en lugar de sembrar dudas como ha estado haciendo todos estos meses es decir una policía

tiene que cumplir los objetivos que toda policía debe cumplir salvaguardar los derechos de la ciudadanía y perseguir a los delincuentes

no ha desaparecido si lo hace bien será valorada y cuando lo ha hecho bien ha sido valorada

lo que yo querría decir sobre este debate que se está llevando a cabo en los últimos meses en relación a la proximidad a la cercanía al carácter público

este departamento está impulsado y creo que no le está haciendo ningún favor a la ertzaintza porque está sembrando dudas insisto la ertzaintza ya es una policía civil

y ha realizado un gran trabajo durante todos estos años y ha desplegado un gran servicio público insisto sobre todo cuando desde instancias políticas

no se les ha dado órdenes diferentes por tanto eso es lo que hay que poner en valor

prever las bajas que vaya haber por jubilaciones y mientras que no haya amortización de plazas sacar a concurso público la cobertura de vacantes otra cosa

tal y como plantea el grupo socialistas vascos ahí lógicamente y dada la situación también de crisis económica en la que nos encontramos tenemos más dudas

gracias señora presidenta buenos días a todos

yo creo que voy a compartir algunas de las apreciaciones que han hecho alguno de los portavoces que me han precedido salvo las del señor arzuaga con la que

por no decir nada estamos como han dicho todos en una semana de debate entorno

el martes en la comisión hablamos sobre ese plan estratégico sobre ese plan horizonte dos mil dieciséis

el modelo policial que defendemos y hoy estamos debatiendo sobre el dimensionamiento de la plantilla de la ertzaintza y yo creo

estos tres temas están absolutamente interconectados porque el modelo policial que se elija tiene influencia en la plantilla y en la cuantificación de la misma el modelo de ertzaintza yo creo que lo compartimos prácticamente todos pero yo

como manifestaba el señor maneiro que todos apostamos por un modelo policial cuyas características sean la cercanía la transparencia la accesibilidad la visibilidad la profesionalidad pero en los que probablemente haya que mejorar como en todo pero yo creo que estos modelos no son nuevos estas características no son nuevas

y que hace que los vascos nos sintamos tan orgullosos de ella

siempre yo creo que la ertzaintza ha sido una policía cercana como dije en la comisión para lo que ha tenido dificultades es y eso lo dijo también el señor iturrate es para acercarse y tengo que compartir con él como no puede ser de otra forma que es muy difícil

detrás de un cristal blindado y es muy difícil estar

cuando uno tiene que negar su condición de ertzaina precisamente para evitar riesgos como decía este modelo que no deja de ser una continuación o una mejora del modelo

y el que expuso la consejera implica más efectivos de seguridad ciudadana a pie de calle y para ello

una reorganización tanto de los medios materiales como de los medios personales

o lo que ha dicho el señor iturrate una optimización de recursos

desde luego este grupo está absolutamente de acuerdo con la optimización de los recursos económicos pero lo que no sabemos es qué quiere decir esa gestión coordinada es verdad que se nos dijo que no iba a significar el cierre de comisarías

de comisarías físicas pero sí prácticamente

ya se intentaron cerrar hace años pero finalmente se consiguió que no se hiciese y por poner un ejemplo que conozco bien que es el de la comisaría de galdakao con una población de casi treinta mil habitantes además presta apoyo

que si reducimos los efectivos si reducimos el servicio que esta comisaría realmente poco estaremos haciendo para esa cercanía de la ertzaintza a la gente a la ciudadanía

que se van a eliminar efectivos de estas comisarías porque cuando lo preguntamos en la comisión no se nos dijo ni sí ni no ni todo lo contrario

de personal y como decía casa mal con esas proximidad que se quiere

una reorganización de la plantilla y en la presentación que se hizo el otro día

cómo se explicaba y se decía que precisamente para sacar efectivos a la calle se eliminaba la brigada de refuerzo la unidad de acompañamientos los ochenta

y a esa reorganización también se le unía otras como la eliminación de la unidad de asuntos internos de tráfico antiterrorista

divisiones yo aunque podamos compartir esa necesidad de sacar agentes a la calle lo que no compartimos

y por poner dos ejemplos no compartimos esa eliminación de la unidad antiterrorista creemos que no debiera desmantelarse porque aunque es verdad que eta ha anunciado el cese

no ha entregado las armas no se ha disuelto y desde luego hay buena prueba de ello en las detenciones que se han realizado

yo creo que hay determinadas conductas que todavía

tan rápidamente no nos parece desde luego adecuado

acompañamiento que venía realizando labores de contravigilancia para mujeres víctimas de malos tratos

de la desaparición de esta unidad se dijo que era para sacar más agentes a la calle yo de todas formas sin perjuicio de mayores explicaciones

que la procedencia de la unidad sigue vigente y

la reorganización del personal está a pesar del poco tiempo que lleva la consejería pues está siendo bastante cuestionada así

y ela se pusieran de acuerdo y abandonaran

en la propuesta que como decía está absolutamente relacionada con este modelo policial la última promoción ha sido la veintitrés y la veinticuatro la promoción número veinticuatro no es que sea una promoción nueva yo no es una ocurrencia ahora

lo que ocurre es que se subordinó a la

de acuerdo con lo establecido en dicha modificación

queremos dar un tirón de orejas al grupo socialista señor unzalu y al anterior gobierno porque

el llevar a cabo esa modificación esa cuarta modificación de la ley de policía y haber podido convocar esa veinticuatro promoción sin embargo no lo hizo

y la compartimos por varios motivos fundamentalmente por los que ha comentado aquí el señor unzalu porque es necesario un rejuvenecimiento de la plantilla porque

caprichoso es además una aspiración largamente perseguida no por el gobierno socialista sino por los anteriores gobiernos

no es que sea un tótem señor iturrate pero una cifra largamente perseguida yo no entiendo ahora que se ha conseguido

no se quiere precisamente consolidar y lo que es cierto es que ahora

este año probablemente ya no los hay pero va a haber menos el año que viene menos y una nueva promoción no se convoca en febrero y se tiene en marzo se tarda un tiempo y teniendo eso en cuenta yo creo

en esa nueva promoción porque además como le decía esta cifra es una cifra que está pactada en la junta de seguridad

cuya financiación se hace a través de un descuento del cupo y lo que nosotros nos preguntamos es

se reduce qué va a pasar con ese dinero se va a devolver

esa es la razón por la que no se quiere alcanzar esa cifra de los

yo realmente creo que como ayer pudimos ver no solamente es una petición de un sindicato sino que creo que es una petición de todo el cuerpo de la ertzaintza el que se cuente con el número de agentes necesario que tengamos una plantilla

elevada y que para eso y dado que como se ha dicho se tarda de dieciocho

que cuanto antes se convoque la ope mejor nada más muchas gracias eskerrik asko

se trata de mantener un número que usted puede estar de acuerdo o no pero aquí no estamos hablando de incrementar el número estamos hablando de proveer las bajas que se van a dar

esto es la cuestión o sea que no confunda usted las cosas o trate de confundir

más detenidamente segunda cuestión la seguridad es un servicio público como cualquier otro servicio público

seguridad se valora cuando hay ausencia de seguridad

público un servicio que necesita la ciudadanía y un servicio tan básico para la ciudadanía como cualquier otro por eso nosotros hablamos de la seguridad que requiere

insisto servicio público que se valora cuando no hay seguridad y en cuanto a lo de la ope

pero nada que ver nuestro compromiso y el compromiso del gobierno del lehendakari patxi lópez fue con un número determinado de ertzainas pactado y negociado en un ámbito determinado como es la junta de seguridad y

también sobre la ope del año dos mil doce

por qué el interés nuestro de convocar la ope señor iturrate

no fue producto de un número que se echa encima de la mesa

usted sabe perfectamente usted sabe perfectamente

nacidas de una reflexión profunda meditada y acorde con esas necesidades de seguridad que tiene la sociedad vasca eso fue lo que llevó a la propuesta del gobierno

y eso fue lo que se consiguió en esa negociación en el ámbito de la junta de seguridad por lo que señor iturrate los necesarios

se convirtieron en los efectivos posibles y por eso yo me he referido a efectivos posibles porque en este caso se funde necesidad con posibilidad

digresión teórica ha hablado de generalidades para no entrar al fondo de la cuestión es más nos ha creado muchísimas dudas sobre si usted realmente defiende

o no lo defiende sí ha dicho usted que esto no puede ser un tótem entonces si los ocho mil no son un tótem qué pasa que cuando en vía cupo

ustedes ya se lo ha dicho la señora llanos van a devolver al estado

pero más importante todavía ustedes pueden

para garantizar la seguridad de la ciudadanía vasca y ustedes además de escamotear fondos

en la conversación del cupo pueden escamotear a la sociedad o

a la sociedad vasca seguridad si no cumplen con el objetivo de mantener los

y ya le hemos dicho que para este año al final del dos mil catorce habrá un déficit de doscientos cincuenta y siete

logro convencer o eliminar las dudas que tiene el señor maneiro al respecto de la ope

se quiso convocar en dos mil doce y luego a ver si me da tiempo de explicar rápidamente el por qué no se hizo la ope desde que se convoca hasta que se incorporan pasan dos años estaríamos hablando de que si se convoca a mediados de este año

por lo tanto en dos mil quince ya se habrá producido un déficit de doscientos cincuenta y siete

setenta y dos jubilaciones más sesenta bajas vegetativas que se deberían de proveer en el año dos mil quince por tanto esa es la explicación no es una explicación

usted sabe que la ope estaba preparada la ope dos mil doce para la vigesimocuarta promoción de la ertzaintza estaba preparada

una medida como era el treinta por ciento de efectivos de mujeres que fue recurrida y que en una sentencia judicial impugnó esa ope y luego para solventar esto para solventar este hecho se incorporó en la modificación cuarta de la ley de policía la posibilidad esta de que haya un número determinado de mujeres ocurre y son razones obvias que usted sabe que en ese proceso

y no quiero ni pensar en qué se hubiera dicho aquí si el gobierno

cuando estaba ya el parlamento disuelto no quiero
ni pensar en lo que nos hubieran dicho todos ustedes muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

behar garela gai honetara gaurko gaira etorrita viniendo ya al tema que hoy nos ocupaba la propuesta entorno

efectivos sin embargo repito nos faltan datos nos faltan elementos

a día de hoy no sabemos ni tan siquiera unas docenas arriba abajo se dice pero realmente en qué números nos estamos moviendo en qué previsiones

de cantidad de agentes nos estamos moviendo entorno a este debate

las funciones las necesidades y las prioridades que debe de

necesario y cuál es la cifra de agentes que se necesitaría para cumplir con esas funciones por qué debemos de dar por buena una cifra

junta de seguridad de la cual no conocemos absolutamente ninguno de sus elementos de decisión

en base a ciertas circunstancias que nos tenemos que empeñar en dilucidar si la ertzaintza está envejecida o se envejecerá en los próximos

ocurriría a la hora de valorar la realización de nuevas promociones y de nuevas incorporaciones tal vez fundadas

enfrentar ese problema sabiendo que sería una cuestión de futuro y hoy estamos hoy estamos ya en ese futuro y ese futuro nos dibuja otras prioridades

usted todavía pueda tocar ciertas teclas en madrid para que

el repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y cuando estos se reduzcan de manera ostensible no dude que apoyaremos con ilusión la ampliación

pero no queremos una nueva promoción en estas circunstancias y por eso como eso queda bien evidente en la enmienda que nosotros hemos planteado será

aclarar al señor maneiro y a la señora llanos que cuando hablamos de reforzar la

el carácter de policía de cercanía de policía de proximidad no estamos rechazando o afirmando que eso no haya existido querer reforzar una ertzaina cercana y de proximidad no es negar que hasta ahora lo haya sido

ustedes como yo conocen y además lo han explicitado ambos ambos utilizando ejemplos que había utilizado yo previamente en comisión para

es como si alguien pretendiese que por enunciar uno el deseo de ser feliz usted qué pretende para los próximos años pues ser feliz si fuese una declaración de infelicidad

el enunciado de los deseos de los objetivos en muchas ocasiones son objetivos de mejora objetivos de mejora continua por lo tanto ni hemos dudado hasta ahora ni lo hacemos ahora ni la consejería de seguridad lo pone en cuestión y desde luego si en algún momento así lo han entendido desde luego abandonen esa

y la fe del partido nacionalista vasco y del departamento de seguridad con la ertzaintza es absoluto

se está insistiendo y por razones partidistas

próximo para estos próximos meses del departamento es más ertzainas en la calle más ertzainas cerca del ciudadano

en los próximos meses en la calle cómo pues racionalizando la gestión reduciendo estructuras no servicios señora llanos

eliminando burocracia reduciendo divisiones no se elimina la unidad antiterrorista ni se desmantela va a continuar se reducen divisiones para reducir la burocracia y los agentes dedicados a tareas administrativas y cuando sea necesario en el momento en que quién tiene que gestionar que es el gobierno

las bajas vegetativas es necesario convocar una ope lo convocará

la portavoz del partido socialista en debate parlamentario en el año dos mil diez

tampoco vamos a utilizar nuestro tiempo en analizar las razones que inicialmente se esgrimieron por el grupo nacionalista para buscar una fórmula de incremento en la ertzaintza y decía

quien tiene la capacidad de autoorganización quien tiene la capacidad de decidir cuándo quien tiene la capacidad de dirección quien tiene la capacidad de organización

consideramos que es el gobierno quien gobierna quien tiene esa responsabilidad pues yo estoy de acuerdo con lo que decía la portavoz del partido socialista ya lo que

es el intento del señor unzalu que se repite por parte de los portavoces socialistas en todas sus intervenciones públicas

del lehendakari lópez como casi la de billy el niño porque decía usted sabe perfectamente me decía a mí

y decía en el colmo del paroxismo lo que le llevó

de dos mil cuatro y usted está atribuyendo al lehendakari lópez

liderado por el señor balza y en el acuerdo

de necesidad de agentes para la protección de los cargos públicos en esa concreta situación en el año dos mil cuatro

y tan es así que en el acta de aquella junta de seguridad señor unzalu se decía la junta de seguridad podrá valorar en el futuro si se dieran las condiciones que así lo aconsejen

de conformidad con los siguientes principios el número dos en atención a un cambio sustancial de las condiciones de seguridad pública especialmente en razón de las necesidades de servicios prestados para proteger a las personas amenazadas por la violencia terrorista de eta porque

no es ni escamotear ni nada parecido señor

ni el partido nacionalista vasco está planteando la reducción en doscientos cincuenta agentes lo que no estamos planteando es hacer de los ocho mil un tótem en este momento

la mayor parte del mandato del gobierno lópez ni tampoco son reales los datos que usted ha dado a finales del dos mil catorce hay

tenemos tiempo tiene tiempo y compromiso el departamento de seguridad del gobierno vasco y el partido nacionalista vasco de mantener los agentes necesarios para el mantenimiento de un eficaz y eficiente servicio público de seguridad en este país siempre hemos estado comprometidos con la ertzaintza lo vamos a seguir estando

por la derecha a ustedes difícilmente les pasaremos difícilmente

yo le decía que compartía poco con usted pero es cuanto más habla la verdad es que menos

ustedes hacen una serie de relaciones que a una no dejan de sorprenderle habla que la tasa de criminalidad es baja

pues no será precisamente baja porque tenemos policía por el número de efectivos que tenemos

la efectividad de este servicio público cuando se bajan las tasas de criminalidad

a ustedes les molesta cualquier policía por eso ocho mil siete mil y tres mil les molesta toda policía

ni la policía nacional ni la guardia civil ni los policías locales ninguna y ustedes lejos de pedir el repliegue lo que podían hacer es pedirle a eta que entregue las armas

que ustedes deberían hacer y de oscura es la junta de seguridad nada hay actas oscuras otras cosas pero vamos

del empleo público negándose a esto lo que están negándose es que a determinados vascos que pudieran conseguir un empleo público en la ertzaintza lo que pasa que ustedes a lo mejor eso les parece una vergüenza estar trabajando en la ertzaintza pues quinientos que probablemente en unos años

nosotros no hacemos autocomplacencia desde luego lo que no hacemos ni haremos nunca es la falta de decencia que usted demostró ayer cuando comparo los quince asesinatos

con otro tipo de sucesos poniéndolos en igualdad de condiciones eso es falta de decencia y desde luego jamás vamos a estar desde luego

no mire la mayor preocupación durante muchísimo tiempo y hasta que eta desaparezca definitivamente

que eta no le matara sabe cuál ha sido no haber sido agredido en la calle y que además esa agresión haya sido jaleada

esa ha sido la máxima preocupación de los ertzainas durante mucho tiempo

señor iturrate los ocho mil agentes

que no que no es que estuviera diciendo usted que había que reducir pero que cuando se aumentó se aumentó por un tema muy concreto mire a mí el señor erkoreka que hoy no está me dijo

con quien sí voy a hablar desde luego es con el señor montoro para que esté

el descuento del cupo depende de los ocho mil agentes si esa cifra no se alcanza

para ver esa cifra del cupo en qué se utiliza

desde luego díganlo ya claramente pero si son necesarios esos ocho mil agentes como se le ha dicho aquí

esa ope el llegar a la

en el mejor de los casos hasta finales del dos mil catorce los agentes de la promoción veinticuatro no estarían en la calle y para ese tiempo desde luego no estaríamos a una decena o veintena

bastante más abajo entonces lo que ocurre es que lo que aquí décimos para determinadas cosas de que no hay dinero

en todas las instituciones y en todos los momentos cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición y yo que he estado en la oposición con el gobierno anterior y con este

les digo que nosotros habíamos apoyado señor unzalu la ley para que se pudiera convocar la ope incluso

para que esa ley se pudiera tramitar y no quisieron porque suponía un aumento presupuestario

no estaban dispuestos a asumir eso sí luego en otras instituciones lo exigen fervientemente nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eztabaida

la votación por puntos de la iniciativa socialista si fuera posible gracias

hitza sí gracias señora presidenta
les anuncio que vamos a ser breves porque hemos llegado a un amplio acuerdo

lo que vamos a hacer es presentar la moción consecuencia de la interpelación que el grupo popular hacía a la señora consejera de desarrollo económico y competitividad referente al próximo programa de desarrollo rural dos mil catorce dos mil veinte dentro de la política agraria común programa de desarrollo rural que es una herramienta importantísima donde tendremos la oportunidad de fijar las medidas

para los próximos seis años y que permitirá afrontar los desafíos estructurales que condicionan

digno en este ámbito y garantizar su sostenibilidad desde el grupo popular entendemos que los principios generales sobre los que debe pilotar

mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural rejuvenecer y fijar su población e incentivar la innovación y el emprendimiento mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria mejorar la productividad y el valor añadido

mejorar la internacionalización de las empresas del medio rural

económica social y territorial promover la unidad de mercado y garantizar la igualdad de trato de los productores se abre una etapa interesante para elaborar este programa de desarrollo rural donde

del consenso entre las administraciones competentes los agentes sectoriales las organizaciones agrarias

entendemos que de otra manera no será eficaz las medidas que contengan ese programa de desarrollo rural por otra parte también en la iniciativa decíamos

debe contemplar medidas objetivas basadas en las necesidades de los productores

a generar economías complementarias a las actividades agrícolas ganaderas forestales y de la madera que sirvan para conseguir una renta agraria digna manteniendo el equilibrio territorial y asegurando una buena calidad

entendemos desde el grupo popular que los anteriores programas de desarrollo rural contenían demasiadas medidas políticas medidas para hacer actuaciones que corresponden a otros departamentos y que en ningún caso deben ser financiadas mediante las políticas de desarrollo rural

a la actividad agrícola y ganadera con el fin de garantizar una renta digna para los productores y también en la

por lo menos uno por territorio hasta ahora solo existe un grupo de acción local en todo el país vasco y entendemos que el reglamento europeo del programa leader que

desde las comarcas para llevarlas a la administración entendemos que con un solo grupo de acción local primero no se cumple el reglamento porque habla de comarcas entre diez mil y cien mil habitantes y la comunidad autónoma

ese volumen por lo tanto entendemos que es más real y más ajustado a reglamento uno por territorio y también nos gustaría y creemos que para que se cumpla plenamente el programa leader que realmente los grupos de acción local

deben cumplir con este reglamento y que más que el cincuenta y uno por ciento de esos grupos de acción local deben ser

de la sociedad de la comarca no de la administración en nuestro caso de verdad que

ese porcentaje de representantes de la administración y no cumple fielmente con el objetivo del programa leader pero bueno esto son medidas que más adelante una vez de que se aprueben

los debates que tienen ahora los trílogos en bruselas saldrán luego los reglamentos y ahí sí que tendremos la oportunidad de profundizar en cada una de las medidas que los reglamentos propongan decir que los grupos

han presentado enmiendas grupo nacionalistas vascos y grupo socialistas vascos enmiendas

podido incorporar y hacer una enmienda de transacción y si quieren les paso a leer la enmienda de transacción en qué consiste tiene

sobre el principio de participación de las diputaciones forales de las acciones de desarrollo rural y de las organizaciones sindicales y profesionales

acordando desde el respeto al ámbito competencial un programa de desarrollo rural que cuente con el máximo consenso institucional y social en euskadi

contemple medidas objetivas basadas en las necesidades de los productores

a las actividades agrícolas ganaderas forestales y de la madera que sirvan para conseguir una renta agraria digna manteniendo el equilibrio territorial y asegurando una buena calidad de vida para sus habitantes el tercer punto

cadenas cortas de suministro dotándolos de contenido y en el cuarto punto

el enfoque leader dentro del marco estratégico comunitario y contemplar para su apoyo un máximo de tres grupos de acción local

a los grupos que no han hecho enmienda yo les animaría a que apoyen la iniciativa porque entendemos que el

para el desarrollo de la actividad y complementar la actividad agrícola ganadera forestal y de la madera y por lo tanto nos gustaría contar con un apoyo

sí gracias presidenta buenos días señorías el agricultura alimentación y medio ambiente puso de manifiesto el pasado

que paralelamente a la negociación comunitaria continuaría trabajando a nivel nacional tanto con las comunidades autónomas como con las organizaciones agrarias para avanzar en la aplicación de la reforma de la política agraria común y consideraba que en ese momento era todavía prematuro establecer cómo se iba a aplicar la política agraria común en españa

que la comisión nos deja poner en marcha para aplicar esa política agraria común por tanto quedan todavía muchas cuestiones que despejar en la aplicación de la política agraria común

todavía muchas cuestiones por conocer y por consensuar con las comunidades autónomas queda por delante como decía la señora lópez de ocariz un importante e intenso trabajo a realizar porque hay mucho todavía por decidir porque la política agraria común tiene en estos momentos demasiadas incógnitas y además está pendiente una cuestión que es complicada si se hace una aplicación de la política agraria común a nivel nacional

se haga una pac a la carta está todavía sin establecer el guión y las pautas de actuación que se determinarán en una conferencia sectorial a convocar ad hoc

esos textos legales y se pueda con conocimiento de causa

a finales de febrero de este año se celebraron unas jornadas con la participación de las comunidades autónomas para debatir la programación de desarrollo rural en el período dos mil catorce dos mil veinte y las conclusiones identifican los principales retos a los que nos enfrentamos si queremos aumentar realmente la eficacia de la programación de desarrollo rural

para desplegar una política de desarrollo rural que mejore el nivel de vida de la población rural favorezca el relevo generacional fomente la innovación mejore la productividad y el valor añadido de los productos agroforestales impulse la internacionalización de las pymes rurales y garantice también

y los socialistas vascos hemos presentado una enmienda a la moción del partido popular cuya esencia y propósitos principales se recogen en la enmienda transada

y además esa enmienda se ha complementado con aportaciones que consideramos muy interesantes en la actual coyuntura

sobre el principio de participación de las instituciones y de los agentes sociales y profesionales afectados

también a las organizaciones sindicales para acordar entre todos respetando el ámbito competencial como no podía ser de otra manera un programa de desarrollo rural en euskadi que se caracterice por haber logrado un amplio consenso institucional y social

del día quince que había una cuestión no menor a dilucidar si ponemos en marcha en materia de política de desarrollo rural un programa nacional y varios autonómicos o si por el contrario solo y exclusivamente programas autonómicos con nuestra enmienda original lo que pretendíamos es que quedase constancia de que los socialistas vascos somos partidarios de que la comunidad autónoma cuente con su propio programa de desarrollo rural porque entendemos

la propia comisión está apostando por un desarrollo rural que permita adaptarse más a las problemáticas específicas de cada región esperamos que las negociaciones entre la comunidad autónoma o las comunidades autónomas y el ministerio se atienda la demanda del gobierno vasco que tal y como nos comentaba en su momento la consejera

en la solicitud de una programación regionalizada y que se adapte a las necesidades de euskadi en este momento ya que nuestra comunidad es decir el país vasco

y necesitamos una política muy adaptada a nuestras necesidades también proponíamos en nuestra enmienda

que se desarrollasen líneas específicas relacionadas con los jóvenes agricultores los pequeños agricultores las áreas de montaña y las cadenas cortas de suministro porque entendemos que hay que promover las medidas de apoyo a los jóvenes para su incorporación al sector

con un programa desarrollado de circuitos cortos y también promover un menú de medidas agroambientales reducido y con un diseño sencillo que se complemente con ayudas realizadas íntegramente con fondos propios y por último proponíamos y se ha trasladado también a esa enmienda consensuada apoyar decididamente el enfoque

estratégico comunitario añadiéndose la posibilidad de un máximo de tres grupos de acción local los socialistas consideramos que en una época como en la que estamos

es en definitiva una política anticíclica que necesita el medio rural y quienes lo conforman es la única política de crecimiento que existe en las zonas rurales con la finalidad de crear empleo favorecer la innovación y la calidad de vida el enfoque leader supone el diez por ciento de los fondos feader y el treinta y tres por ciento de la inversión que realiza la comunidad autónoma

ayuda a emprendedores y microempresas este enfoque va a tener un gran protagonismo en el diseño que se realiza de la nueva política agraria comunitaria dentro del marco estratégico común

en la que se proponía por parte de este grupo que el programa desarrollo rural contemplase tres grupos de acción local uno por cada territorio consideramos que la enmienda de transaccional elimina la rigidez que se planteaba en principio

establecer el máximo de tres grupos de acción local los socialistas valoramos muy positivamente la estructura actual con un solo grupo de acción local y pensamos que ha dado

no solo porque en los últimos cuatro años nos ha permitido estar en cabeza de las comunidades autónomas en ratios de ejecución solo aragón estaba a nuestro mismo nivel habiendo recibido las felicitaciones de las misiones enviadas por la comisión europea

momentos para afrontar los retos de la nueva pac la propuesta que se hacía obligaba desde el principio a triplicar estructuras en tiempos de crisis y además el hecho de existir tres programas distintos puede a nuestro modo de ver o pudiera a nuestro modo de ver dificultar su ejecución en los primeros años y podría suponer

de hecho hay experiencias en este sentido que están llevando a las comunidades autónomas a mirar el modelo de euskadi como son

por eso entendemos que es más adecuado o es más acertado dejar el tema abierto en la convocatoria pública para la selección de los grupos de acción local responsables

y por último mostramos nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado con esta transacción

hoy aquí establecidos más las líneas estratégicas que se van a seguir y el trabajo a realizar por todos los agentes que intervienen en el mundo rural se logre la elaboración

que despeje las incertidumbres de hoy que impulse el empleo y que nos permita afrontar los desafíos estructurales que condicionan la sostenibilidad y el logro
de un nivel de vida digno en el medio rural muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

y parecería razonable dar una visión rápida y a poder ser didáctica y por lealtad a los que se han quedado a escuchar

para que en vez de desconectar de este debate consigamos atraer mínimamente su atención y así entre todos

porque los lenguajes críticos alejan los raciocinios y por tanto alejan de las problemáticas estamos hablando básicamente de programación y de financiación más bien de cofinanciación europea en el marco de programas plurianuales de la unión europea de manera similar

pues bien la programación en el ámbito agrario primera política comunitaria hay que recordarlo se hace a través del fondo llamado feader que simplificadamente se divide en dos grandes áreas

que son las ayudas directas que llegan a los agricultores y ganaderos

o bien a proyectos que impulsan el desarrollo agrario como por ejemplo a las industrias alimentarías

los que se dedican estrictamente al desarrollo de economías alternativas a las agrarias en esas zonas

del programa y dentro de ese enfoque leader como ya se ha dicho aquí las autoridades comunitarias

la existencia de los llamados grupos de acción local que son los que recogen las diferentes sensibilidades del mundo rural para actuar como colabores de los gestores en este caso el gobierno vasco

y que debe cumplir con la normativa dictada en forma de directivas y reglamentos para continuar con la didáctica sería bueno que esta cámara conociese que los diferentes reglamentos y directivas que regularán la futura programación en euskadi están todavía en borrador

para que todos nos hagamos una idea de lo que es un pdr valga unos pocos datos del que actualmente esta vigente y que comenzó el dos mil siete

este mismo año esta programación que inicialmente contó con ochenta millónes de euros de la unión europea se ha visto suplementada recientemente

millónes de euros para alcanzar en definitiva en lo que el período dos mil siete dos mil trece va a suponer una inversión pública total

correspondiente de cuatrocientos noventa y dos millónes que totalizan a final de este año y durante todo el período de programación un montante de setecientos dieciséis millónes de euros

una atenta mirada sobre esta programación comunitaria clave para el mantenimiento modernización y desarrollo de nuestro sector agroalimentario y el mundo rural el pdr realmente la

esto requiere sin lugar a dudas en primer lugar un trabajo coordinado y cohesionado entre las cuatro administraciones agrarias cuestión que hace no muchos días ya explicó la consejera arantxa tapia aquí mismo cuando señaló que el trabajo con las diputaciones forales

de la toma de posesión de este gobierno así mismo una planificación de este tipo requiere de un trabajo con los diferentes agentes y subsectores cuestión que también quedó aclarada

el trabajo está avanzado pero llegará un momento en que no se pueda profundizar

están todavía en borrador como ya he dicho recuerden que todavía es muy reciente la aprobación de los recursos financieros

esto lo digo a nivel europeo a nivel estatal quedan todavía demasiadas cosas por resolver incluso todavía está debatiéndose la posibilidad de detraer hasta un cinco por ciento de los fondos del primer pilar de las ayudas directas al sector

en esta cámara la transacción realizada

de pacto por parte de todos los grupos y que quiero agradecer no deja de ser una ratificación de lo expuesto hace un par de semanas por la consejera de desarrollo económico y competitividad

y contando con la participación de los sectores beneficiarios de las ayudas que el pdr contempla ayudas objetivas para cubrir las necesidades de calidad vida del sector agrario su renovación sectorial la potenciación de mercados locales y cadenas cortas y que también deberá contemplar ayudas a la industria alimentaria que entendemos es el verdadero estabilizador y estructurador del sector agrario

estructurador de zonas rurales un apartado en la resolución que solicita al gobierno la posibilidad de que pueda haber hasta tres grupos de acción local colaboradores con la administración tradicionalmente en este tema se ha trabajado con un grupo mendinet desde hace veinte años y no hay queja de ese funcionamiento porque además recogen en su seno a la totalidad de asociaciones de desarrollo rural de euskadi

a través de un concurso público como se debe hacer reglamentariamente se abra la posibilidad de otras organizaciones colaboradoras lo que podría incrementar la diversidad que no necesariamente

tampoco falto a la verdad si señalo que en términos generales

y resaltada como modelo de gestión del pdr y particularmente

por otras comunidades autónomas de diferentes colores por cierto

del ministerio de agricultura español la necesidad de que se apruebe en la conferencia sectorial correspondiente

al menos en lo que se refiere a euskadi por un lado en el primer pilar de ayudas directas disponer de plena autonomía para fijar las distintas acciones

a los diferentes subsectores es lo que propondremos por otro lado en lo que al plan de desarrollo rural se refiere seguiremos demandando un programa regional propio

y superpuesto que invada una vez más nuestra capacidad de acción política o de gestión son demasiadas la veces en que utilizando argumentos trapaceros

en este caso aprovecha las normativas comunitarias lógicamente abiertas a multitud de posibilidades

pero que aquí están meridianamente claras al menos para nuestro grupo

no obstante y para finalizar merece congratularse de nuevo y agradecer la disposición de los grupos a un pacto sobre las directrices que debe seguir la futura programación

en lo que debe ser las bases o los aspectos básicos con los que debe iniciar el proceso de elaboración del programa de desarrollo rural estamos pidiendo en la moción

agrarias los agentes sociales del sector

y entendemos que esta cámara también tiene un papel importante en ese pronunciamiento son

el objeto de la moción y el objeto de la enmienda de transacción que estamos debatiendo

luego a la hora de valorar los aspectos de gestión

esta comunidad autónoma siempre ha contado con un programa de desarrollo rural propio por lo tanto creo que esta vez no será de otra manera no sé por qué algunos grupos dudan de que pueda ser así pero también tenemos que pensar

una unidad de mercado no podemos garantizar igualdad de trato a los productores

diecisiete tipos de ayudas a los productores por lo tanto habrá algunos elementos que tienen que ser básicos y generales otra cosa es aspectos concretos a determinadas producciones en determinados ambientes pero bueno como esto va a ser

porque dará de sí yo les agradezco el apoyo a esta enmienda de transacción y muchas gracias

que hoy nos hemos puesto de acuerdo y que nos hayamos puesto de acuerdo no es un tema

hemos acordado y parece ser por lo escuchado por unanimidad del parlamento los directrices de programación para los próximos cinco años de las políticas de desarrollo rural en euskadi que conllevarán

unos ochocientos millónes de euros y que concitará gasto público del gobierno vasco las tres diputaciones la unión europea y seguramente

ha dejado asuntos en el disco duro del ordenador de cada uno de los grupos de hecho

escuchando a los que me han antecedido en la palabra se puede observar

ponernos de acuerdo en los mínimos comunes ese es el fundamento del pacto y una demostración del interés y del apoyo del parlamento a la elaboración

como frontispicio de las políticas agrarias en nuestro país en los próximos cinco años

porque en general no ignoramos lo mismo yo añadiría que por lo mismo tampoco sabemos lo mismo ni deseamos lo mismo pero solo desde la perspectiva aforística de conversar

aquí tenemos reflejado la unanimidad en las directrices y orientaciones de una política presupuestaria sectorial a medio plazo si hemos sido capaces de esto por qué no seguimos por similar camino para alcanzar pactos y políticas presupuestarias pactadas en las que tan necesitados está este país

ondorioak necesitamos un sector público fuerte en cualquier coyuntura para asegurar los servicios básicos de la ciudadanía creando empleo digno y de calidad pero una coyuntura como la actual con un sector privado lastrado por las deudas y con una falta de financiación

el sector público tiene que ser el motor de la economía pero con políticas de incentivación de la economía que pongan a las personas en el centro de las mismas

decir lo dicen pero no lo llevan a la práctica recortan en personas quieren ahorrar en personas sí

han cuantificado ustedes en diez millónes de euros lo que supone este decreto que acaba con las treinta y cinco horas semanales en el sector público ustedes pretenden ahorrar a costa de quienes nada han tenido que ver con la crisis financiera sin embargo la deuda pública por inversiones injustificadas sí que ha tenido que ver sin embargo si miramos al intento de presupuesto que su gobierno presentó

para los trabajadores y trabajadoras del sector público y trescientos setenta millónes para un tren de alta velocidad ustedes lo han cuantificado diez millónes

euros lo miramos por otro lado

que pueden servir para crear empleo para ofrecer unas condiciones dignas de trabajo y para no deteriorar más los servicios públicos

les permita flexibilizar el límite de gasto

podrán elegir invertir en personas o invertir en cemento bukatzeko izan zirelako gara garelako izango dira

de nuevo buenos días señores consejeros eh bildu en su moción nos plantea básicamente dos cuestiones por un lado pide que este parlamento inste al gobierno vasco a cumplir la ley y en concreto la ley diez barra dos mil de carta de derechos sociales

propone que este parlamento inste al gobierno vasco a derogar el decreto

por el que se modifican las condiciones laborales del personal de la administración pública vasca lo cierto es que en la interpelación de hace quince días que nosotros seguimos con mucha atención eh bildu recordaba al gobierno vasco que a través de un decreto

empeorando como consecuencia de ello sus condiciones laborales y empeorando por ello los servicios públicos

a partir de ahí eh bildu critica esta decisión del gobierno vasco

como logro histórico alcanzado en la mesa general de la administración

a partir de ahí insiste en que empeorar las condiciones de los empleados públicos implica empeorar los servicios públicos y en que

repartir ese trabajo lo cierto es que en esa interpelación que nosotros seguimos detenidamente con mucho detalle el gobierno vasco el señor erkoreka responde básicamente lo siguiente por un lado que ese decreto fue negociado en la mesa general de la función pública pero

el señor erkoreka olvida señalar algo ciertamente importante y es que la negociación acabó en desacuerdo lo cual no puede ser considerado en absoluto como un tema menor por otro lado que ese decreto incorporó además de la jornada laboral otra serie de aspectos que el señor erkoreka recordó

el teletrabajo el régimen de la incapacidad temporal los contratos de relevo

y finalmente el señor erkoreka es decir el gobierno vasco respondía que este gobierno vasco debe cumplir las normas básicas del estado pero obviando voluntariamente que el real decreto del gobierno de españa

al gobierno para auto organizarse y que permite y le habilita para negociar y seguir negociando en la mesa general de la función pública

en esa interpelación yo quiero insistir que la propia redacción del real decreto del gobierno de españa permite sin mayores problemas que euskadi se auto organice el real decreto

cuál es el asunto aquí fundamental yo creo que aquí el asunto fundamental es que el partido nacionalista vasco el gobierno vasco está encantado de seguir

del gobierno del partido popular yo creo que esta es la clave del asunto sobre el cual estamos hablando que el gobierno vasco que el partido nacionalista vasco está en seguir la senda de los recortes del gobierno del partido popular obviando que tenía margen y tiene margen para organizarse cumpliendo ese real decreto del gobierno de españa y que en todo caso aunque hubo negociación esa negociación acabó en desacuerdo conviene también recordar que este decreto de este gobierno

de carta de derechos sociales y que por lo tanto lo pertinente habría sido que este gobierno hubiera traído la correspondiente modificación de la ley para que fuera este parlamento quien pudiera modificarla además este decreto no solo empeora las condiciones de trabajo de los empleados públicos sino que trae digamos que accesoriamente

una serie de resultados lesivos para la propia gestión de los servicios públicos menos personal supone menos servicios públicos cuando estos están fundamentados en actividades de carácter personal y más carga de trabajo supone menos calidad en la prestación de servicios y por tanto peores servicios públicos especialmente en

incide en la política de recortes sociales y ajustes y en cargar la carga de la crisis en quienes no tienen la culpa de ella y por lo tanto sigue la senda

de españa y lo hace ya digo voluntariamente una cosa es tratar de alcanzar una administración pública más eficaz y más eficiente y tomar medidas para que esto

y otra cosa bien distinta es impulsar recorte sobre recorte y todo por buscar un ahorro económico más bien minúsculo en fin nosotros nos hemos opuesto nos oponemos y nos seguiremos oponiendo a los recortes sociales que continúa impulsando el gobierno de españa desde la reducción del sueldo de los funcionarios

pasando por las reducciones a la dependencia la reducción de las pensiones o la reforma laboral entre otras muchas que podríamos citar y nos hemos opuesto

a todas las medidas parecidas semejantes de

que haya podido impulsar el gobierno vasco tanto el anterior como este

una enmienda de transacción con el grupo socialista que consta de cuatro puntos en primer lugar

mostramos nuestra disconformidad con el real decreto ley veinte barra dos mil doce de trece de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad

de medidas injustas y contraproducentes para salir de la situación de crisis económica en la que nos encontramos y en concreto mostramos nuestra disposición contraria

para salir de la crisis tenemos datos recientes en españa a día de hoy

y en euskadi tenemos ciento sesenta y cuatro mil setecientos parados por tanto la conclusión es evidente

el gobierno de españa y también el gobierno vasco no sirven para salir de la crisis sino que lo único que están sirviendo es para ahogar a los ciudadanos y que el desempleo y el paro siga creciendo en el segundo punto instamos al gobierno vasco a lograr la máxima eficacia y eficiencia del sector público de euskadi esto debe hacerse para que ofrezca unos servicios públicos de calidad

de bienestar sin recortes ni ajustes ni medidas o pronunciamientos que cuestionen de forma gratuita como se ha venido haciendo en los últimos tiempos la indispensable

realizan es decir una cosa es tomar medidas para lograr la máxima eficacia y eficiencia del sector público y otra cosa es no hacer otra cosa que

sobre recorte y tercer punto instamos al gobierno vasco a declarar su compromiso con la plena vigencia de la ley diez barra dos mil de la carta de derechos sociales y finalmente en coherencia instamos al gobierno vasco a derogar

para personal funcionario estatutario y laboral de la comunidad autónoma de euskadi

absolutamente injusta y contraproducente para garantizar los mejores servicios públicos posibles y para salir todos juntos de la situación de crisis en la que nos encontramos

egun on guztioi egun on sailburu jauna el objeto del debate hoy yo creo que es la apuesta por los servicios públicos o no

y sobre todo el hito histórico que supuso la conquista social de las treinta y cinco horas

laboral llevábamos mucho tiempo escuchando es verdad

no solo en españa sino en muchos otros países diciendo que la reducción de la jornada

se decía también que la deslocalización de muchas empresas estaba causada entre otras razones por este factor cuando la ecuación en nuestra opinión es otra

más empleo es el debate que a veces se da entre trabajar menos para trabajar todos que en el fondo es el reparto del empleo a ganar menos para trabajar todos y también últimamente el trabajar más para seguir trabajando las treinta y cinco horas supusieron

lo podemos compartir calidad de vida tiempo para el ocio para la conciliación y con ellas se consiguió también

la organización y competitividad de numerosas empresas y se facilitó también la creación de mucho más empleo y nos encontramos hoy en este debate cuando el gobierno vasco ha roto de manera unilateral los acuerdos existentes entorno a esta cuestión

pero hay que recordar que la carta social que se aprobó en el año dos mil en esta cámara fue una iniciativa que vino de fuera de la cámara que vino de la ciudadanía de los agentes económicos y sociales

ese acuerdo amplio y paradójicamente en la enmienda que el partido nacionalista vasco nos presenta afirman que continúa vigente

no tiene mucho sentido el decreto ciento setenta y tres barra dos mil trece y qué han hecho con este decreto porque a mí modo de ver lo que ustedes perseguían

escasos porque según los informes jurídicos que acompañan al decreto no llegan a once millónes de euros de los cuales hay que decir que la mayoría nueve millónes

millones que por cierto podían obtenerse de una mejor gestión de los hospitales de una mejor gestión de la compra pública de un mayor uso de genéricos en fin de pensar las cosas antes en vez de ir a lo fácil que es esta medida y vuelvo sobre el acuerdo

que fue un acuerdo para fortalecer el empleo público y los servicios públicos y son precisamente estos últimos los que peor parados salen con este decreto y el gobierno sabe y los responsables de la función pública saben que la jornada laboral en euskadi

y que la traslación automática no es posible aquí los festivos se computan como trabajados en españa se computan como fiesta en euskadi si trasladaríamos el real decreto estaríamos hablando de mil setecientos horas anuales por lo tanto

con este decreto no nos pueden alegar que ustedes están cumpliendo el real decreto de rajoy porque no lo están haciendo están escudándose en el decreto y poniendo como excusa su cumplimiento para someter a nuevos recortes a los trabajadores públicos y en un tema que además

no es baladí la jornada de treinta y cinco horas y tratando de vender como novedades

han hecho ahí una labor de prestidigitación con la mesa sectorial de lakua que bueno han salido los sindicatos a corregirles vendiendo como novedades

fue una iniciativa nuestra aprobada en la última mesa sectorial de lakua

de la administración general era una reivindicación muy vieja de los trabajadores de lakua y nosotros en esa mesa sectorial la acordamos con ellos y fue un acuerdo firmado ampliamente por diversos sindicatos ustedes han hecho ahí un totum revolutum

han dado buenas palabras a los sindicatos tanto a la mesa general como a la mesa sectorial sobre otras cuestiones

las externalizaciones etcétera cuestiones que vienen de antes que todavía no se han visto reflejadas en ningún decreto

encima ocultan lo que es en realidad su verdadera motivación y yo creo que lo que se tenía que haber hecho aquí es explicar al gobierno de españa que una vez más

anual se computa de manera diferente y que además euskadi es una comunidad autónoma que cumple con la estabilidad presupuestaria es decir somos una comunidad saneada una comunidad que cumple con el objetivo del déficit que tiene los deberes hechos

y por lo tanto creo que eso es lo que tenía que haber hecho el gobierno y no aplicar

porque además los funcionarios y los laborales vascos han hecho muchos esfuerzos en los últimos años les hemos pedido esfuerzos

y los han hecho porque son trabajadores que están comprometidos con su labor que no son ajenos a la situación económica que se vive en la calle y que como el resto de trabajadores de otros sectores económicos arriman el hombro y ahora con esta medida todos los trabajadores públicos pierden pero es verdad que hay algunos actores que salen especialmente dañados como es el de sanidad y además es especialmente sensible porque está en contacto permanente con la ciudadanía

nuestra sanidad se va a ver profundamente perjudicada por esta aplicación de la ampliación de la jornada de trabajo

hemos presentado esta enmienda a la iniciativa presentada por eh bildu la hemos acordado con upyd para la que pedimos el apoyo del resto de grupos de la cámara en la cual pedimos no solo la derogación del decreto por injusto e innecesario

de la carta social y una reprobación a las medidas que está adoptando el gobierno de españa y que no nos llevan más que a una mayor recesión y a un mayor desempleo
como así se ha visto hoy con los últimos datos que hemos conocido sobre el desempleo en españa y en euskadi nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

hurrengoa esaten du bere laugarren puntuan en cuanto a la cuantificación anual

esaten du la jornada laboral anual equivalente a la jornada treinta y cinco horas semanales se corresponde con un total máximo

ekimenak sindikatuekin adosten por lo tanto

el sector privado está haciendo un gran esfuerzo y el sector público también

donde los propios trabajadores que a la vez son dueños de la empresa han disminuido el sueldo y han aumentado su propia jornada laboral

de trabajo efectivo junto con la posibilidad de elegir el tipo de jornada continua partida o mixta es algo muy codiciado por cualquier trabajador en cuanto al marco negociador entendemos que sí ha habido negociación

el marco negociador no se ha limitado a la jornada laboral de las treinta y cinco horas semanales ha habido otras cuestiones

existentes anteriormente también se han propuesto medidas para la generación de empleo en todo momento el objetivo de este gobierno es mantener la plantilla existente en la administración pública así se ha manifestado una y otra vez

no se vulnera la esencia del acuerdo del año dos mil berretsi beraz ez gatozela bat eh bilduk aurkeztutako mozioarekin

el decreto ciento setenta y tres barra dos mil tres de cinco de marzo por el que se establece la jornada de trabajo anual

de la administración de la comunidad autónoma del país vasco determina la jornada

este real decreto se ajusta a los acuerdos existentes y se ajusta cómo no a la normativa básica de los empleados públicos establecida en el real decreto ley veinte barra dos mil doce de trece de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad y además así aparece en la justificación el real decreto ley veinte barra dos mil doce de trece de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad

para hacer viable más pronto que tarde la recuperación económica y estar preparados para comenzar una senda de crecimiento estable en nuestro país

la destrucción de empleo a los desequilibrios existentes se ha unido la crisis de confianza en los mercados financieros

es fundamental para superar esta situación y comenzar la

a los mercados extranjeros es necesario

que tiene españa la estabilidad el crecimiento la competitividad

un gobierno no puede permanecer impasible es necesario pasar a la acción porque ya hemos perdido demasiado tiempo señorías

y este gobierno las está tomando algunas de ellas son muy duras de tomar pero eran absolutamente necesarias para hacer frente a esta situación tomar medidas

este real decreto ley que luego fue posteriormente convalidado en el congreso

en él se recogen medidas relacionadas con la consolidación fiscal para cumplir los compromisos de la unión europea y también más reformas estructurales

la senda de crecimiento es necesario que nuestras finanzas públicas sean sostenibles y estables en el tiempo es necesario adoptar medidas de racionalización en la administración

es necesario reducir el déficit vemos que el déficit público se ha reducido del nueve por ciento al seis coma noventa y ocho por ciento que había una desviación importante y esto ha permitido avanzar en la credibilidad de las cuentas públicas conseguir financiarnos en el exterior y más barato

de la recuperación económica en definitiva señorías flexibilizar la economía española para hacerla más competitiva y estar preparados para crecer y crear empleo

es ejercer su responsabilidad e intentar arreglar las cosas aunque tenga que tomar decisiones complicadas que es lo que está haciendo de españa si muchas de estas decisiones se hubieran tomado antes quizás no hubiéramos estado ahora

en definitiva hemos perdido demasiado tiempo

más yo creo que usted señor maneiro ha hecho un discurso absolutamente simplista y ya el colmo de la demagogia es instar al partido nacionalistas vasco y digo el colmo de la demagogia por parte de upyd es instar al pnv

upyd y menos mal que últimamente nos estaba diciendo que upyd lo que nunca iba a hacer era renunciar a sus propios principios señor maneiro y a la señora mendia le diría que parece que el partido socialista tiene memoria frágil no se acuerda de las decisiones que ha tenido que acatar

y cuando ella era concretamente consejera de justicia y administraciones públicas

cuando el gobierno socialista rebajó el sueldo a los funcionarios un cinco por ciento y este gobierno el gobierno de patxi lópez cumplió esa decisión sin rechistar

no había invasión de autonomía y no se hizo absolutamente nada lo que hoy he visto aquí señora mendia es que ya ustedes casi hacen un discurso más nacionalista que los propios nacionalistas yo creo que también en aras a esa demagogia pretenden ir más allá pero bueno mire cada uno pues tiene su recorrido

murrizketak aplikatzea y usted lo ha dicho que no se va

pero no solo es eso la reducción del empleo y la destrucción del empleo

trabajadores y trabajadoras interinos que pueden quedarse sin empleo

con este decreto a lo que el señor erkoreka llamó daño colateral eso también es destrucción de empleo

euros recortando en estos momentos en trabajadores y en trabajadoras gainera

hori y también le digo que la administración pública debe ser el referente en las condiciones laborales no al revés no el sector privado referente para la administración pública las condiciones laborales que se tienen que aplicar con decretos como este se abre la puerta a la precarización laboral también en el sector privado

ere encubierto y no solo traemos señora garrido la situación de los trabajadores y las trabajadoras del sector público hemos traído aquí también

la situación de lo trabajadores y trabajadoras de corrugados del grupo san eloy

en que situación están esos trabajadores y esas trabajadoras

a los trabajadores y trabajadoras del sector público no son privilegiados son clase trabajadora trabajadores

contra trabajadores y no lo van a conseguir azkenik esatea orbegozo jaunari

en la comisión de la administración pública sacó el tema del ayuntamiento de donostia yo he traído aquí el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal del ayuntamiento de donostia san sebastián lo voy a dejar aquí

firmadas con todos los sindicatos en el año dos mil doce

aplicando en el año dos mil trece no hay que faltar a la verdad cuando no se tienen argumentos

para defender un gobierno sea y tú más en gipuzkoa y tú más en donostia y encima con argumentos falsos ahora bien para acabar

les voy hacer una propuesta estos ataques y otros muchos que vendrán recentralizadores y que recortan derechos laborales y sociales

euskal herria bildu buscará cómo desobedecer cuando lleguen inhabilitaciones que pueden llegar dónde va a estar el partido nacionalista vasco

conjunta con euskal herria bildu a lo que imponen desde madrid
esa es la pregunta y espero su respuesta eskerrik asko

sí muchas gracias presidenta señora garrido que para variar

no se ponga usted nerviosa lo cierto es que ustedes

disfrutar siempre con los recortes sociales tanto con los recortes sociales que impulsa el gobierno central

vasco cuando no hay necesidad para que se impulsen esos recortes sociales y tampoco existe obligatoriedad de que este decreto sea como efectivamente

no existe esa obligatoriedad sin embargo ustedes en cuanto observan que hay un gobierno que impulsa recortes sociales enseguida salen a defenderlo porque de paso

señora garrido los principales problemas que tiene españa son el desempleo el incremento de la pobreza la desigualdad los recortes sociales

estos son los principales problemas que tiene españa y desde luego el gobierno de españa no está resolviendo ninguno de ellos al revés los está empeorando

cada viernes es una muy mala noticia para el conjunto de los ciudadanos como efectivamente estamos comprobando con los datos recientes que hoy hemos conocido en relación con el paro

que el conjunto de españa necesita sino está haciendo justo lo contrario impulsar todas aquellas medidas que están llevando al país y a los ciudadanos a la ruina esa es la realidad de los hechos decía usted que el gobierno de españa no puede permanecer

casi más valdría que estuviera impasible pero no se trata de que el gobierno de españa esté

aquellas medidas necesarias no para hundir el país ni para hundir a los ciudadanos sino para rescatarlos de la crisis económica en la que nos encontramos y a día de hoy no ha tomado

necesitan los ciudadanos y la coherencia y los principios de upyd aquí y en el congreso de los diputados es oponernos a estas ineficientes e ineficaces y contraproducentes e injustas medidas que está impulsando el gobierno de españa por lo tanto en nuestra opinión lo que debe hacer este

es cumplir la carta de derechos sociales debe retirar el decreto debe seguir negociando con los representantes de los trabajadores por supuesto debe cumplir la normativa básica del estado por supuesto que sí siempre lo hemos defendido pero sin obviar que en este caso

tiene el gobierno capacidad suficiente para auto organizarse sin dejar de cumplir la normativa básica y eso es lo que nosotros queremos que haga este gobierno que cumpla la normativa básica pero que la cumpla en su integridad y que utilice

auto organización para proteger los servicios públicos esto es lo que defiende upyd por lo tanto hay que cumplir la normativa básica pero en toda su integridad euskadi tenga capacidad para auto organizarse sin incumplir esa normativa básica que lo haga en lugar de escudarse en lo que hace el gobierno de españa porque en el fondo está de acuerdo con esas medidas de recortes que el gobierno de españa

el gobierno vasco y debe en cualquier caso mejorar los servicios públicos

impulsar medidas que vayan en la línea de ganar eficacia y eficiencia por supuesto que sí pero lo que no tiene que hacer es impulsar recortes gratuitos que

absolutamente necesarios por lo tanto el gobierno vasco debe mantener y proteger las condiciones laborales de los empleados públicos y debe abandonar la senda de los recortes sociales gratuitos esto es lo que nosotros

con esa transaccional que hemos pedido que hemos firmado con el grupo socialista en coherencia con los principios y las ideas que nosotros siempre hemos defendido gracias